muchas gracias señora presidenta señorías buenos días el grupo popular se ha abstenido en esta votación

ha sido el sentido de nuestro voto evidentemente compartimos como bien ha dicho la proponente que la corrupción es una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía en todo el estado y en esta comunidad autónoma

y en esta cámara más porque además últimamente y hoy seguiremos con estos asuntos se están juzgando casos de corrupción que salpican a todas las formaciones políticas y a todas las instituciones por lo tanto hay que tomar medidas cada uno como considere más oportunas la doctrina nos dice que tenemos dos opciones la vía judicial endurecer las penas

y por otra parte la creación de oficinas como la que se está proponiendo hoy en esta proposición de ley del grupo eh bildu nosotros somos más partidarios de dar más medios

reforzar su independencia defender su independencia y dejar que ellos hagan su trabajo no porque estemos en contra de iniciativas como esta y de oficinas como

sino porque desconfiamos por la experiencia de que el resultado sea positivo estas oficinas ya funcionan en otras comunidades autónomas en otros sitios la verdad es que recientemente

frutos y pensando en los casos de corrupción más cercanos que tenemos yo sinceramente no veo

que salpican a todo el ámbito político y a todas las instituciones qué función podrían tener estas oficinas yo realmente no la veo no confío en ello

a fiscales crear una fiscalía anticorrupción específica para nuestras instituciones dotar de medios económicos a la inspección de hacienda a la policía judicial

sí que son tipos delictivos ya vigentes y conocidos por todos por lo tanto

para mucho y luego la experiencia qué nos lleva a pensar que efectivamente

nos puede llevar a que sea una oficina completamente inútil otras instituciones tenemos también creadas y defendidas por este parlamentario con un importante poder de investigación y de ejecución como el tribunal vasco de cuentas públicas que ejerce sus funciones y al frente del mismo

la responsable de la segunda mayor institución del

y en otros cargos de responsabilidad política es el que preside el órgano que tiene que investigar su función la de la

todos los ayuntamientos del territorio histórico de bizkaia porque tendría que abstenerse de todos porque ha tenido relaciones absolutamente con todos es decir si creamos una oficina de este tipo y ponemos a una persona que luego tiene

en el tribunal vasco de cuentas públicas y que es lo que entiendo que podría ocurrir en oficinas como estas a pesar de que la elección de esas personas de esos responsables

en la que por supuesto nos ofrecemos a trabajar con ustedes para que esas personas responsables por mucho que estén elegidas por esta cámara al final podemos encontrarnos con situaciones como la que ya les he citado y de verdad sinceramente creo que para los grandes casos de corrupción

y defender la independencia de fiscales de jueces y de tribunales y dotar de medios económicos y materiales

no obstante desde luego ofrecemos ya desde este momento la posibilidad de trabajar para en lo que sea posible mejorar el texto que por lo que se ha visto en la votación va a trabajar esta cámara una vez que

es favorable a que este parlamento valore la creación de una oficina de buenas prácticas y anticorrupción y lo es por varias razones

y de hecho esta propuesta recoge literalmente propuestas ya llevadas a cabo en otras comunidades

cuando tuvimos oportunidad de liderarlo y que se han mantenido hasta la fecha y que nos pusieron a la cabeza en materia de transparencia y que desembocaron en prácticas administrativas que se han mostrado efectivas para atajar prácticas que pudieran derivar en corrupción

porque no es novedoso el impulso de una normativa exigente en materia de control de la actividad pública menos todavía cuando se hace casi un calco de lo que han venido haciendo comunidades vecinas en este caso de la de navarra

antes de ayer en la comisión de educación ante una representante del parlamento de navarra que nos explicó en detalle las características de la agencia navarra nos parece pertinente en este debate un reconocimiento del camino que se abrió también en euskadi

evaluación sobre lo que ha funcionado y lo que no en otras comunidades que no debe ser ajena al trabajo que tiene por delante esta ley que se nos plantea

somos por tanto favorables a la tramitación de esta ley por sus intenciones aunque en su definición nos parece que se aleja del proyecto más ambicioso que creo que ya estamos trabajando

la creación de una agencia específica que como es conocido en otras comunidades no ha sido el instrumento más eficaz en lograr lo que aquí se nos propone y no es una posición que tengamos ahora

se nos planteó la creación de una agencia específica para la vigilancia de actividades administrativas dijimos y así es como se está trabajando en la ponencia de la ley de transparencia que era más

el debate que nos propone bildu y al que accedemos por supuesto pasa por que hagamos una reflexión entre todos

o si es preferible que las funciones que aquí se nos plantean sean redistribuidas por razones de eficiencia y de eficacia entre entidades ya existentes

las diferentes comisiones de ética pública existentes en distintas instituciones y la propia fiscalía el grupo socialista entiende por tanto que la propuesta que hoy sigue su cauce

en el caso socialista así como desde la que hemos impulsado los grupos parlamentarios que apoyamos al ejecutivo actual la tarea que tenemos ahora es de casar

que sea realmente eficaz que es el objetivo fundamental entiendo de la iniciativa eficaz para el fin que se dice perseguir eskerrik asko pastor jauna

egun on guztioi bueno muy brevemente voy a pasar a explicar la razón por la que mi grupo

y es que creemos que la sociedad vasca ha tomado conciencia en los últimos años del grave problema que supone la corrupción y el clientelismo en euskadi es claro hasta qué punto la corrupción quebranta los derechos más básicos de las personas lo hemos visto en el caso de las ope dopadas de osakidetza recientemente

además conlleva una pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones y en quienes las lideran se necesita una voluntad política fuerte y constante para luchar contra la corrupción a todos los niveles es necesario por ello adoptar

de combatirla y es preciso también actualizar la legislación vigente para implantar nuevos mecanismos de control y represión de las actividades ilícitas

la corrupción desde los adoptados por el convenio de naciones unidas contra la corrupción hasta las decisiones marco y reglamentos emitidos por el consejo de europa a este respecto trasparencia internacional ya propuso una serie de grandes retos afrontar

la reducción de cargos de libre designación la mejora de legislación y la regulación de los lobbies o la incorporación

aunque sin duda es necesario mejorar la normativa y endurecerla

que la corrupción nace y crece siempre al margen de la ley o bien fuera de ella o bien por una aplicación parcial o interesada de su contenido precisamente por ello la fiscalización de la actividad pública y privada debe ser más independiente

a criterios de transparencia clave para luchar contra este problema a ello hay que unir la necesidad de que se cuente con un sistema judicial

los juicios de corrupción en una eterna carrera o una fiscalía anticorrupción con medios suficientes creemos también que la participación ciudadana es uno de los medios más eficaces que existen para exponer y combatir la corrupción política y como tal debe ser protegida y fomentada por los poderes públicos véase como ejemplo las tres personas denunciante de las filtraciones de los exámenes de osakidetza por nuestra parte nada más

pero ante todo procuraremos que la creación de esta herramienta no suponga una excusa para no seguir trabajando en mecanismos que atajen el clientelismo o la corrupción en general y que no acaben convirtiéndose en un instrumento carente de actividad o en definitiva como bien usted ha dicho

porque lo que sí es necesario es que la rendición de cuentas y estructuras de auditoría seguimiento control y justicia funcionen adecuadamente mila esker

en la construcción de un marco de integridad institucional un marco exigente que actúe anticipadamente

y la cuestión aquí es cómo hacemos viable ese modelo preventivo

razonable y lo que hemos de someter a debate y discusión es si el modelo concreto que se propone en la proposición es el más adecuado para lograr tan loables fines primero porque se trata de un modelo a nuestro juicio no suficientemente contrastado y que no ha supuesto una mayor eficacia o efectividad en el uso de fondos públicos allí donde se ha desplegado tal y como se pone de manifiesto en el acuerdo adoptado por el gobierno vasco

y está sometido hoy a debate en el congreso de los diputados a propuesta del grupo parlamentario de ciudadanos y los resultados son cuestionables

o frustrantes en el peor por lo tanto no se trata de adoptar miméticamente lo que en otros lares no funciona o funciona mal

de los mandatos y medidas que se dibujan en el texto que se somete a consideración se pueden integrar perfectamente en el dispositivo jurídico

vigente en nuestra comunidad autónoma contamos con un dispositivo potente para promover la integridad impulsar la transparencia y prevenir y combatir la corrupción

algunas de las ideas y preceptos de esa proposición están siendo hoy objeto de debate y transacción por los grupos parlamentarios en la ponencia de la proposición de ley sobre transparencia y participación ciudadana por tanto es aconsejable la debida coordinación entre las exposiciones que emanan

más teniendo en cuenta uno de los principios inspiradores de esta ley que es la colaboración de la oficina de nueva creación con otros organismos y entidades de derecho público

el informe del gobierno da cuenta de una panoplia de organismos y entidades que están al servicio de las administraciones públicas vascas para impulsar la transparencia

son nueve instancias diferentes y diferenciadas y no voy a citar todas hoy aquí pero van desde

hasta el ministerio fiscal pasando por el ararteko entre otros como se ha evidenciado en otras latitudes entendemos que la proliferación de organismos y entidades que pueden suponer

no asegura una mayor aptitud y utilidad en la batalla contra prácticas no deseables

por lo tanto sin entrar en algunas de las medidas de fondo que se proponen algunas discutibles y otras no tanto creemos que el encomiable espíritu de las mismas puede incardinarse o incorporarse a ese marco de integridad institucional ya vigente en nuestra comunidad eskerrik asko

egun on guztioi la violencia sexual hacía niñas niños y adolescentes es una gravísima vulneración de los derechos

y por supuesto reiteramos nuestro más absoluto rechazo contra cualquier expresión de violencia hacía la infancia y la adolescencia el abuso sexual infantil es una de las múltiples formas de violencia el abuso sexual al igual que la explotación sexual que la pornografía infantil la trata de bienes de explotación de sexual el turismo sexual son formas de violencia que atentan contra la integridad

contra el bienestar y desarrollo de niñas niños y adolescentes los abusadores y esto debe quedar muy no son enfermos no son elementos aislados con patologías únicas son ciudadanos compañeros de trabajo entrenadores profesores vecinos padres abuelos

el cura de la parroquia del barrio el entrenador de baloncesto el señor que nos cruzamos todas las mañanas en la panadería en el autobús o en el metro

afortunadamente en las últimas décadas y gracias en gran medida se ha producido una progresiva visibilización de la violencia en el ámbito doméstico

eso quiere decir que nos estamos quitando la venda de los ojos es un fenómeno

transcultural que ninguna sociedad está libre de estas violencias

sobre principios y prácticas principalmente adultocéntricas son la expresión de una sociedad adultocéntrica y patriarcal

de poder cosificar y mercantilizar los cuerpos de la infancia la adolescencia y las mujeres es muy importante que tengamos en cuenta esto último porque como ya hemos dicho lamentablemente no se trata de hechos aislados cometidos por personas enfermas hay que huir de las falsas soluciones simplistas

en los últimos meses hemos tenido conocimiento a través de los medios de diversos casos de violencia sexual son solo una pequeña muestra de lo que realmente está sucediendo

estos casos han tenido gran resonancia en los medios de comunicación han generado alarma social e indignación en gran medida hemos percibido

que esta grave vulneración de derechos también sucede en nuestro entorno más cercano en realidad la invisibilidad y la consiguiente perplejidad de muchos ciudadanas y ciudadanos es comprensible cuando constatamos una y otra vez que faltan datos e información sobre el fenómeno además llevamos años avanzando a ciegas según todas las especialistas sin una foto real de la dimensión de esta vulneración de derechos desde elkarrekin podemos venimos trabajando a través de diferentes iniciativas más y mejor sobre la materia y también impulsando medidas e iniciativas diversas especificas tratando de impulsar políticas para afrontar esta dura realidad hace más de un año invitamos a comparecer en este parlamento

de abusos sexuales en la infancia visibilizando violencia y también invitamos a

análisis de la situación de la violencia hacía niños niñas y adolescentes en euskadi desafíos y recomendaciones en las comparecencias nos confirmaron que el abuso sexual es un fenómeno más abundante del que normalmente aparece reflejado en las estadísticas por su opacidad

de su incidencia a estas dificultades

hay que añadir que en el país vasco el último estudio de prevalencia realizado sobre el tema data de mil novecientos noventa y cinco en este estudio

entrevistadas afirmaban haber sufrido abuso sexual han pasado ya veintitrés años está claro que nos faltan muchos datos

una iniciativa para impulsar cambios concretos y culturales que vayan abriendo camino para continuar avanzando

de toda violencia hemos trabajado para lograr el acuerdo entre todos los grupos hemos sido muy flexibles y hemos buscado

llegar a un acuerdo de toda la cámara aunque para ello hayamos tenido que renunciar a nuestros máximos y también es cierto que hemos tenido que renunciar a explicitar

no entendemos por qué no se ha querido por parte del pnv

es importante tenerla reflejada en ella y en consecuencia que no se nos olvide porque es un caso lamentablemente muy bochornoso en muchos aspectos

en primer lugar manifestamos nuestra total solidaridad con todas las víctimas de violencia sexual en la infancia y adolescencia

que están denunciando y visibilizando esos casos de abuso sexual

de derechos como parlamento nos comprometemos a impulsar todas las medidas que sean necesarias para avanzar en la erradicación de la violencia sexual hacia niños

a todos a que prevalezca el interés superior de niñas niños y adolescentes principio que tiene que ser especialmente tenido en cuenta en todos los casos en que se denuncie una violencia sexual un claro ejemplo de lo que esto significa fue la decisión tomada por un club deportivo que en cuanto tuvo conocimiento de posibles abusos priorizo la protección de todos los niños sobre la protección de los adultos o de la propia institución este parlamento

denunciar y proteger a denunciantes y víctimas facilitando en todo momento el esclarecimiento sanción reparación integral de todos los casos que se denuncien en los centros educativos vinculados a ella asimismo

en la adopción de medidas que ofrezcan garantías de no repetición

muy adecuada por parte de la iglesia ante unas denuncias sobre abusos

reacción aislada y que se consolide este camino de ahora en adelante y otra aportación que hace que esta iniciativa y acuerdo para mejorar la atención a estas

todos los protocolos de inspección sobre las acciones de los órganos de dirección de los colegios de todos los colegios ante las denuncias y condenas de abusos sexuales en sus centros

de medidas de adecuación del procedimiento correspondiente de infracciones y sanciones dentro del marco normativo referido de los colectivos implicados

es injustificable que la dirección de un centro educativo y de su máximo responsable dejen sin protección juzguen públicamente

esto no se puede volver a repetir y realmente hoy no hemos podido dar más

pasos firmes en este sentido pero hay que continuar trabajando para que se termine la protección de instituciones que fomentan valores de segregación exclusión

el caso de gaztelueta pasará a la historia como un claro ejemplo de lo que un centro educativo no debe hacer jamás

abusos son necesarios cambios profundos en el marco normativo con necesarias herramientas para afrontar mejor esta vulneración de derechos y avanzar hacia una sociedad

violencia decir que esta iniciativa que hoy estamos debatiendo aquí

con el caso que ha marcado y continúa marcando un hito en la lucha de la violencia sexual

antes de terminar quiero detenerme

a la víctima y a la familia de este caso manifestamos todo nuestro apoyo

y como no puede ser de otra manera nuestro más sincero reconocimiento por vuestra persistencia y porque nunca

justicia y reparación y destacamos que siempre ha sido desde el respeto con muchísima discreción y sin alarmismos han luchado

por abrir caminos para su caso y para todos los casos que se producen y puedan ocurrir de aquí en adelante gracias sinceras a la víctima por su valentía

y a todas las personas que os han acompañado aprovecho también para manifestar nuestra indignación

que nuevamente ha puesto en duda la palabra del menor víctima de violencia sexual poniéndose al lado del agresor y apuntándose a la corriente del yo no te creo

decir que nosotras sí te creemos que elkarrekin podemos y la coalición compuesta por podemos

y por nuestra parte tenéis todo nuestro respaldo y toda nuestra justicia eskerrik asko eskerrik asko arana

legebiltzarkideok egun on desde el grupo popular también queremos manifestar

un mensaje muy claro en relación a las situaciones casos de violencia

en la infancia y en la adolescencia que es la tolerancia cero nuestro máximo rechazo y contundencia en la actuación para

gai honi buruz decía que no es la primera vez que debatimos sobre esta cuestión la lacra y las lamentables situaciones de

a menores y que además este tema ha sido objeto de acuerdos en este parlamento en concreto voy a citar dos

en la comisión de derechos humanos en ese

creación de una ponencia específica para estas cuestiones no se creó la ponencia pero sí se logró un acuerdo también en la línea del acuerdo anterior al que he hecho referencia del veintisiete de abril del dos mil diecisiete este fue en la comisión de derechos humanos hemos tenido también oportunidad los grupos de conocer informes informes exhaustivos

y algún otro al que voy hacer referencia también sobre esta cuestión informes completos que nos ofrecen una radiografía exacta

lamentables situaciones como decía es importante lanzar un mensaje y en la mayor de las posibilidades que sea unánime de tolerancia cero y máxima contundencia estas situaciones y sobre todo también involucrar y desde las instituciones públicas tomar todas las medidas que fueran necesarias para

de violencia el abuso sexual es una de las múltiples violencias que se ejercen hacia la infancia y adolescencia y podemos además

y sobre todo yo le doy valor a los informes a los que acabo de hacer referencia porque

que en muchos casos y en la mayoría de los casos permanecen ocultas y que son difíciles de determinar en este sentido también me gustaría citar y por

informes que ya hemos tenido ocasión de estudiar y de analizar de forma exhaustiva en este parlamento un informe también de la fundación anar que ayuda a los niños y adolescentes en riesgo en donde

una radiografía muy exacta de evolución de los tipos de violencia de las consecuencias de la violencia del perfil del agresor del perfil de la víctima de

desprecio humillaciones el ciberacoso y me parece también un dato interesante al que también hacía referencia el informe de eraikiz kolektiboa en donde se señala el informe

situaciones de violencia se producen en distintos ámbitos que no se circunscriben a un ámbito concreto y a mí me parece importante que esto lo tengamos muy presente o sea que estas situaciones se pueden producir

distintos este informe cifraba que el noventa por ciento de los casos se produce en el entorno familiar este tipo de situaciones

que mencionaba de la fundación anar habla de que en el ámbito estatal la mayoría también de los casos

un veintiocho por ciento de estas situaciones

y un siete coma cinco por ciento en los ámbitos de las nuevas tecnologías cuestión que también creo que está cobrando una importancia

inadecuado entre las consecuencias que el informe de esta fundación destaca

de violencias señala el aislamiento bueno la principal es la ansiedad luego el miedo síntomas depresivos problemas psicológicos agresividad rabia y aislamiento y que también en uno de cada tres casos se producen lesiones

los menores y los adolescentes creo que en el país vasco tenemos herramientas efectivas para combatir estas situaciones pero sí que es cierto y en la línea de los pronunciamientos ya alcanzados en esta cámara y tanto en la comisión de derechos humanos como en sesión plenaria pues es necesario

o fomentar mejor dicho su desarrollo e instar al gobierno vasco actuaciones

adolescencia y en este sentido nosotros en nuestra enmienda

mandatos en relación a este observatorio ya hay un

creemos que es necesario fortalecer y también todos aquellos protocolos en el ámbito educativo dirigidos a la prevención y actuación en situaciones de este tipo que también es necesario reforzar en definitiva creemos que es necesario un compromiso efectivo ineludible de los poderes

y sobre todo dirigido a proteger la integridad y la intimidad de los menores también creemos importante actuar en el ámbito educativo y en el origen aunque

dónde puede estar el origen de este tipo de violencias pero por eso creo que es importante apelar nuevamente a una educación en valores en el respeto y en la dignidad

y el respeto a la persona con actuaciones concretas a las que hacíamos referencia en nuestra enmienda que tienen que ver con la prevención sensibilización

por los grupos nosotros no nos vamos a posicionar en contra creo que es importante que desde hoy de esta cámara salga un pronunciamiento sí no se hubiera gustado

puntos concretos en la línea de que este tipo de violencias se producen en todos los ámbitos y que no se puede discriminar

a un ámbito concreto con mayor énfasis que a otros pero bueno

que es importante que haya un pronunciamiento de esta cámara en línea también

que ya ha habido en este parlamento sobre este asunto besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido

gracias presidenta y buenos días a todos el abuso sexual infantil es una de las formas más graves

y conlleva efectos devastadores en la vida de los niños y las niñas que lo sufren estas prácticas han sucedido siempre han existido y la verdad que no son nuevas

cuando por un lado se ha reconocido su impacto y las consecuencias negativas que tienen en la vida

y por otro lado se ha reconocido al niño como sujeto de derechos el abuso sexual infantil implica la transgresión de los límites íntimos y personales del niño o la niña como la imposición de comportamientos de contenido sexual por parte de una persona hacia ellos y ellas

de la política y por supuesto también de la política vasca son nuestros niños los que están siendo agredidos con consecuencias a veces irreversibles en su vida y en la de su entorno y en todos y cada uno de los contextos en los que los niños

de ahí que los ámbitos a la intervención en la protección de los niños contra este tipo de violencia

a los ámbitos educativo sanitario y policial así como el legislativo y de políticas públicas

cuyo cumplimiento íntegro pedimos en esta enmienda transaccional y es lo que ratificamos entre otras cosas nuevamente los grupos políticos firmantes para su cumplimiento en ámbito de la competencia de las instituciones vascas porque esto es un fenómeno a veces invisible silencioso complejo

donde la información escasea y las tasas de incidencias son superiores a los que se cree

porque según nos informan los expertos no se dispone de estudios y los que hay aunque son metodológicamente correctos

y eso les hace caer en las estimaciones donde obviamente cabe la equivocación

porque estamos ante una violencia que no es pública y que no acostumbra a dejar evidencias físicas lo que muchas veces complica su detección externa se incrementa invisibilización del abuso sobre todo cuando la víctima es un niño es una violencia cercana

disminuye la violencia ejercida por extraños en la calle pero permanece e incluso puede incrementarse la violencia de cercanía más difícil de identificar

esta violencia no responde a perfiles no hay rasgos distintivos de las víctimas o de los abusadores sin estereotipos definidos no hay nada que determine el que un menor o una menor sufra abusos sexuales cualquiera puede ser una potencial víctima pero compartimos los hoy intervinientes y sobre todos los expertos que nos informan

en que hay factores que coadyuvan a que existan estructurales y de riesgo

que una protección que nunca tuvo pero supeditada a la protección y tutela de otras personas

pero a la vez son invisibles y se mantienen al arbitrio de los mayores que no siempre son garantía de amparo

que van destinadas a la visibilización del problema y su desplazamiento de lo privado a lo público visibilización la experiencia sufrida condición sine qua non para iniciar cualquier proceso que lleve a superarlo primero para detenerlo si aún se está produciendo y segundo

el abuso tiene que dejar de ser un secreto entre persona abusada y la abusadora

y la dimensión pública es una visualización social dimensión pública que puede ser

y que nunca más tiene que ser ocultada ni bajo el silencio familiar ni en los confesionarios de la iglesia

rigor y servicio público situar por encima de todo la verdad visibilizarla no hacer caso de los que puedan mirar hacia otro lado

acabar con los procedimientos judiciales insensibles al interior superior del niño y la niña incrementando la obligación de denuncia de todos aquellos lugares donde se puede conocer el abuso

haber sufrido abusos sexuales en el ámbito familiar pudieran verse privados de derechos fundamentales y procesales

como una consideración primordial hasta aquí las explicaciones del partido socialista a un tema de una forma más general en lo que tiene que ver con los abusos sexuales a niños y niñas y adolescentes pero el partido socialista de euskadi no quiere quedarse en esas consideraciones generales y quiere hablar del caso gaztelueta que entendemos

no pueden hacer como que no ha pasado nada ni quedarse de brazos cruzados

incumpliendo los protocolos de actuación ante la denuncia de abuso sexual y defendiendo al condenado por abusos después del fin del procedimiento judicial aunque sabemos que todavía queda

las autoridades de este colegio puede que no hayan tenido responsabilidad no hayan sido declarados responsables administrativa o penalmente de la situación de abuso sexual que sufrió el menor

éticamente repugnante e indigna de unos responsable educativos en esta sociedad vasca mayoritariamente comprometida contra la violencia en la enmienda transaccional hay compromisos vinculantes para que los poderes públicos desde el judicial al gobierno con un objetivo

la garantía de que en nuestro país y en todo el país en todos los ámbitos pero especialmente por el asunto que nos ocupa los centros escolares públicos privados y concertados

existen protocolos de actuación es verdad pero también es cierto que no siempre se cumplen es más puede ser incluso que además de eso después de existir condena de los abusos sexuales denunciados

que los órganos de dirección del colegio incurran en una actitud o comportamiento público vergonzante e incluso negador de lo que una sentencia judicial ha recogido por todo lo dicho

por supuesto mostrando nuestra solidaridad el apoyo y respeto a la víctima

reconociendo la necesidad y exigencia de actuación de los poderes públicos existen herramientas se aprueban protocolos pero hay que continuar trabajando con un objetivo claro y es que

por último creemos que es necesaria una legislación que obligue y sancione es fundamental el compromiso ético de la sociedad que no puede mirar hacia otro lado y es exigible para trabajar
para que las víctimas y sus familias no sufran el desamparo después de lo sucedido nada más muchas gracias eskerrik asko

el parlamento vasco insta al gobierno vasco a seguir implementando y desarrollando

en los distintos ámbitos competenciales ante presuntos delitos de abusos sexuales a menores de edad así como a otros relativos a desprotección maltrato y acoso

se insta a que en los casos en los que la normativa vigente así lo exija el gobierno vasco se persone como acusación

la situación política de cataluña nos interesa nos interesa porque siempre y en la mayoría de los casos nos afecta o nos puede afectar y nos preocupa porque pensamos que lo que sucede en cataluña

en cataluña no es lo mejor para buscar soluciones ni en cataluña ni en euskal herria en relación a un pueblo

que quieren construir una democracia basada en el respeto a la voluntad de su ciudadanía eta horregatik ekarri dugu

porque pensamos que los jueces ningún juez ni como personas individuales ni colectivamente tienen asignada u otorgada una función que parece que han asumido que es la defender la patria y la unidad de la patria porque que no pueden utilizar sus funciones para extralimitarse de las mismas y para hacer

fuera de esas funciones estén en el sitio que estén en la escala judicial porque la función de ejecutar y de juzgar no les permite tomar una postura activa en persecución de conductas que

única y exclusivamente a actuaciones políticas porque la función instructora en la jurisdicción penal no puede tener ni olvidarse nunca de las garantías jurídicas y procesales en todos los procedimientos

aplicar de manera extensiva los delitos al servicio de unas decisiones políticas porque los jueces no pueden actuar con criterios de oportunidad y esto ha quedado bien claro en todas las actuaciones de persecución que han hecho con

activando órdenes o desactivándolas en función de los intereses y de las resoluciones judiciales en los diferentes países porque tampoco se puede elegir

atraer de manera arbitraria la competencia y todo esto ha quedado bastante en evidencia en las resoluciones que han dictado

horiek kontutan hartzen direla por qué décimos esto y por qué creemos que es tan importante también este punto que hemos planteado y que hemos acordado con el grupo parlamentario nacionalistas vascos porque los últimos días estamos asistiendo

escalada dialéctica importante contra cataluña a los habituales llamamientos que hacen algunos partidos de la derecha española al ciento cincuenta y cinco y que están en boca de todos ellos durante todos los días hemos visto con preocupación y vemos con preocupación esas cartas que el gobierno sánchez ha enviado al gobierno catalán y vemos con preocupación

nos habla de diálogo nos habla de solución pero no nos pone encima de la mesa ninguna propuesta concreta ni ningún plan en ese sentido y se limita a hacer

sin hacer nada más que eso un llamamiento al diálogo eta gainera hori guretzako

eta doaz esateko que cataluña españa y que españa manda en cataluña y yo así es como veo ese consejo de ministros que se va a hacer mañana en cataluña y además me parece que tampoco puede ser muy extraño elegida se hace el día veintiuno de diciembre el mismo día que el año pasado se votó el mismo día que se eligió un gobierno independentista en cataluña y

en los que por el otro lado estamos oyendo por el lado de la derecha que se tiene que aplicar el ciento cincuenta y cinco se elige ese día hombre igual no se hace con una idea de

hori egiten no nos podemos olvidar de que la huelga de hambre es una denuncia es una denuncia que plantean las personas que están

y están señalando además o quieren señalar con esta huelga de hambre el carácter político del proceso al que están siendo sometidos

que se van a ver entre la sala segunda del tribunal supremo casi con seguridad no se van a respetar sus derechos y piden al tribunal constitucional que atienda sus demandas es verdad que la sociedad catalana les está pidiendo y ayer conocimos una carta que dejen esta huelga de hambre

que están haciéndola hasta ahora por lo menos y que llevan mucho tiempo en esa situación eta

de quien está sometido a una situación de prisión por criterios ni jurídicos sino por criterios ejemplarizadores colectivos y esto es otra muestra más de que el proceso judicial

obtiene en su base unas connotaciones políticas y una especie de finalidad

gabonak dira y a la mayoría de la gente en navidad

el olentzero a algunos los reyes magos seguramente los reyes magos yo siendo del partido popular me lo pensaría un poco porque hay uno que se llama baltasar

y les hizo una pequeña faena cuando destapó algunas cosas de la corrupción

que le pida las cosas a quien quiera al olentzero a mari domingi o a quien quiera yo

para que dejen pacíficamente que cataluña decida su futuro

y déjenle que decida y si no hacen ninguna de las dos cosas espero que les traiga carbón del bueno besterik ez eskerrik asko

de abordar la grave crisis territorial que atenaza al estado

una lado la de bildu y pnv con una línea

de los partidos del proces y por otro la del partido popular y del pse que se aferran al no por el no de una forma más o menos explícita

un pp cada vez más derechizado y con el miedo a que se les cuele por la derecha a

o la contraria lo mismo se les ve como la semana pasada amenazando con sustituir la labor

que ofrecer una reunión de sánchez con el gobern que a nosotros nos parece muy bien que se reúna sánchez con torra nos parece lo normal en un estado democrático y de derecho

y que lejos de una noticia debería de ser algo normal más si cabe cuando las situación es de tensión y de conflicto no pero lo que se necesita son menos anuncios y gestos y más hechos

y decididos para reconducir un conflicto político que necesita soluciones políticas y no judiciales eta hemen dago

honi buruz en todas las enmiendas que elkarrekin podemos hemos registrado

presentado aquí hay un elemento que nosotros repetimos una y otra vez que es la referencia de organizaciones de derechos humanos como amnistía internacional o mecanismos

como el alto comisionado de los derechos humanos y porque hacemos esto por qué

porque en un momento en que las posiciones de los partidos se polarizan en bloques y en frentes o

o porque en un momento en el que las instituciones como el poder judicial

un poder independiente y respetable lo que hacen es convertirse

de uno de esos bloques y estando en ese momento nosotros estamos convencidas de que es más necesario

neutrales e independientes que pueden ofrecer algo de luz

político y judicial y desde luego si elkarrekin podemos afirmamos rotundamente que la prisión preventiva de los líderes del proces es absolutamente excesiva

lo afirmamos porque así lo dicen organizaciones independientes de derechos humanos

del delito de rebelión o con las faltas graves de garantías que se están viendo en las instrucciones del caso es evidente que la polarización el alineamiento de unos y otros partidos de uno frente al otro hace

y sus opiniones no son menos importantes obviamente pero desde luego a ojos de una buena parte de la ciudadanía no son una referencia objetiva

estas instituciones independientes en buena medida si la ciudadanía vasca y elkarrekin podemos también

es excesiva y exacerbada que el delito de rebelión es desproporcionado o que no se están respetando las garantías judiciales exigibles

o a torra o al señor egibar o a la señora goirizelaia es porque se lo oyen decir a amnistía internacional a human rights watch o al alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos

como dijo mi compañero jon hernández en el debate sobre la vigencia de la constitución la izquierda vasca coincidimos con euskal herria bildu y con pnv en el diagnóstico

por eso no hemos firmado la transacción pero como repetiré al terminar la intervención

se propone que el parlamento vasco haga de observador de derechos humanos en juicio en el juicio a los líderes del proces que es probablemente el punto en que menos de acuerdo estamos en la transacción que se ha firmado

para ser creíble para ser eficaz para ser útil a las personas que potencialmente pueden ver vulnerados sus derechos fundamentales debe ser independiente debe ser neutral y debe ser objetiva

y no miembros de pnv bildu o cualquier miembro de este parlamento

que dice zapatero a tus zapatos y nosotros

de transar un texto en estos términos pero es verdad que no ha sido posible entonces si tienen bien a votar por puntos la enmienda coincidiremos en algunos de ellos

bien yo voy a empezar con coincidir en algunas cosas con la señora goirizelaia

de réplica y usar un tono mesurado a la hora de plantear las iniciativas de cada cual creo que en poco más vamos a coincidir

de que el proponente de esta iniciativa tiene otra en la que proclama la separación de poderes y reprueba a un magistrado que ha dado una opinión sobre lo que hacemos los políticos

creo que es bastante conocida hay quien busca que esta cámara evalúe a los jueces en función de si le dan o no la razón y este parlamento no está para esto ya hablaremos cuando toque al respecto lo que hoy se nos propone es sinceramente un despropósito más

unívoca de las cosas de nuestra sociedad de la sociedad española de la sociedad catalana y un despropósito más en esta cadena interminable

diciendo cada uno lo que nos da la gana porque este parlamento va a votar que este parlamento

sentenciando por adelantado que el sistema judicial que los profesionales de la justicia a la que usted con los que usted conoce perfectamente no son garantistas de nuestros derechos

la que cada cual tengamos tiene un valor superior en un estado de derecho al procedimiento tasado que hay para acusaciones y defensas pruebas y testigos y peritajes y por mucho que alguno se quiera colocar por cierto no me dirijo ya a la señora

y colocarnos a los socialistas en el mismo lado sin matices que el partido popular pues creo que es sinceramente poco creíble a ojos de todo el mundo

no son ciertas como cuando ustedes pretenden arrogarse esto de la izquierda vasca cuando hace cuatro días nos decían que aquí no hay ni izquierda ni derecha sino los de arriba

quizás es porque como estamos en navidad y llega el olentzero igual quieren ustedes que se lo regale

pero es que además este parlamento va a volver a demostrar que hay una mayoría de esta cámara a la que esa perversión que dan ustedes por descontada del sistema judicial

de lo que se habla es de su único pensamiento el independentista nunca jamás he visto que hayan promovido observadores

en juicios en los que se valoraba la vulneración de derechos sociales eso es como de segunda clase para ustedes hoy confirmamos una vez más lo que ya sabemos que hay una mayoría en esta cámara que está obsesionada con su causa independentista y es cierto que olvida de nuevo a la mitad de la sociedad catalana también de la vasca aquella que se sintió abandonada por sus representantes políticos por cierto en cataluña

que envidia esos procesos que han dividido por cierto hasta extremos sumamente peligrosos a la ciudadanía y que además quiere dar calor a quienes lo defienden mi grupo entiende

de los que se acusan y podemos entender e incluso compartir las críticas a una situación de prisión provisional y podemos entender que se hagan todas las reflexiones que se quieran sobre las decisiones que adoptan los tribunales sobre los más que reprochables mecanismos de utilización policial de creación de una policía política que se han ido conociendo lo que nos parece inadmisible es el empeño por querer demoler ese espacio que acordamos hace cuarenta años hace poco tuvimos aquí una iniciativa en ese sentido tratar de

que nos permite estar hoy en este parlamento y nos parece incomprensible también el empeño en que en ese empeño encuentren siempre un aliado

gracias a ese espacio que pactamos hace cuarenta años el grupo socialista no va a participar ni por activa ni por pasiva en esa estrategia

de diálogo de negociación de pacto de pluralidad y de legalidad

que es la que hacemos en nuestra enmienda y vamos a seguir haciendo lo que esté en nuestra mano para que desde nuestros gobiernos no haya ni la más mínima tentación

en sus decisiones de arrastrarse hacia el muy peligroso camino al que el independentismo catalán ha abocado al conjunto de aquella sociedad a la que sinceramente nosotros

jordi turull josep rull raúl romeva

en definitiva los tres cuatro puntos que vamos a someter a votación y que se van a aprobar son los siguientes el parlamento vasco

que realiza el estado español en el proceso judicial contra dirigentes independentistas de cataluña y constata que el denominado documento cosidó que algunos han calificado supone la quiebra absoluta

porque descubre con absoluta transparencia la estrategia de dirigir el poder judicial desde instancias políticas controlando la sala segunda del tribunal supremo desde atrás y presidiendo la sala sesenta y uno con el objetivo político de descabezar líderes del soberanismo catalán

esto ya lo subrayó y lo elevó a condición estratégica en su día soraya sáez de santamaría el parlamento vasco

a las y los independentistas catalanes constituyen además de un disparate jurídico un despropósito social y político el parlamento vasco manifiesta que la judicialización de la política lejos de ofrecer soluciones enquista bloquea y dificulta las mismas el conflicto político derivado de la relación entre el estado español y cataluña debe encontrar

por vías políticas y democráticas por ello el parlamento insta a los distintos poderes del estado español a respetar al pueblo de cataluña a las personas que lo integran sus derechos individuales y colectivos y las decisiones

adopten sobre su futuro político el parlamento vasco exige

la inmediata puesta en libertad de carme forcadel jordi sánchez

jordi turull josep rull raúl romeva

y finalmente el parlamento vasco acuerda estar presente en las sesiones de la vista oral a celebrar ante la sala segunda del tribunal supremo mediante la delegación designada al efecto para lo cual solicita a la presidenta de la cámara la realización de las gestiones oportunas

con la decidida voluntad de tratar con el rigor y con la seriedad que merece esta cámara una iniciativa que hoy nos presenta a la limón bildu y el partido nacionalista vasco que

ese respeto y desde luego no está a la altura de lo que una cámara de estas características una cámara como esta merece

el ingenio en la intervención ha leído por dos veces la

y yo voy a hacer algo parecido pero resumiendo no se preocupen porque me parece muy relevante lo que el partido nacionalista vasco

han acordado ustedes afirman que en españa se instrumentaliza la justicia el partido nacionalista vasco afirma que

el partido nacionalista vasco afirma que los delitos que se pretenden imputar a las y los independentistas catalanes sic porque no es a los independentistas sino a los independentistas que se habían saltado la ley constituyen un disparate jurídico

auspiciado e impulsado por bildu y también

exigen el partido nacionalista vasco y bildu en una cámara legislativa exigen al poder judicial

de graves delitos ustedes se erigen por lo tanto no solo en legisladores que ya lo son

sino que se erigen como abogados se erigen en fiscales

ustedes son la ley no solo la hacen no solo tienen la potestad constitucional de aprobarla

y tienen la osadía de venir a esta cámara y decirnos qué es y que no es legal y decirle a los jueces a los magistrados a quién tienen que poner en la calle o no

de lo que nos enfrentamos que hay políticos que además en ese mismo texto

y lo dicen en esta tribuna con pretendida y con una impostura seria

que no creemos en la democracia y que no creemos en la separación de poderes cuando seguidamente le dicen a los tribunales lo que tienen que hacer quién decide qué es delito o qué no es usted señor egibar de verdad usted viene a esta cámara a decirnos qué es delito y qué no es

quién debe de ser juzgado y quién no de verdad esto es lo que defiende el partido nacionalista vasco claro que es lo que defiende el partido nacionalista vasco

regímenes constitucionales de las democracias liberales de occidente me atrevo a decir no solo de este país sino de los que nos rodean es que vivimos en conflicto vivimos en la discrepancia política claro que sí porque hay gente que opina de una manera y gente que opina de otra

se articulan de herramientas para facilitar que esa discrepancia tenga un cauce busque puntos de encuentro de convivencia entre diferentes

lo hemos resuelto ya hace mucho tiempo a través de la ley

para que no sea la voluntad del señor egibar o la de la señora goirizelaia

hay normas hay leyes que debatimos primero en parlamentos aprobamos y cuando alguien se la salta hay tribunales que son los que aplican la ley

porque aunque parezca el discurso dominante esto no es así la ley

y de eh bildu la ley su cumplimiento su observancia o no depende de lo que los tribunales deciden en función de lo que hemos aprobado previamente en las cámaras legislativas esto básicamente se llama separación de poderes

desarrollada en españa y yo lo debatimos esto también en este parlamento

dan de bruces con la ley con los tribunales y con su aplicación mire

o cualquier otro dirigente político me podría pasar a mí le adelanto que no va a pasar nunca le podría pasar a usted

en otros momentos de la historia cuando un dirigente político resulta que ante requerimientos por ejemplo del tribunal constitucional no solo no los cumple sino que decide posar con cinco resoluciones del tribunal constitucional

en cualquier país democrático que se respeta a sí mismo tiene consecuencias

aquí sale satisfecho de haberse conocido cinco resoluciones del tribunal constitucional las pongo

no esto tiene consecuencias si hay determinados individuos

deciden subirse a un coche de la guardia civil pintarlo llenarlo de pancartas y alentar a la turba

evidentemente como ustedes comprenderán aquí y en cualquier país moderno tiene consecuencias

vaya usted a biarritz o a san juan de luz defienda la independencia de euskal herria

magnetófono en mano pintado previamente llenado de pancartas previamente el coche de la policía nacional francesa exija usted

porque la ley como ha quedado claro es usted y es la turba

a ver qué le pasa señora goirizelaia en la época más complicada

en la época más terrible de la violencia callejera ustedes se cuidaban muy mucho de alentar movimientos en el otro lado de la muga en iparralde en el país vasco francés se cuidaban muy mucho

o eran perfectamente conscientes lo que suponía alentar determinados comportamientos ilegales eso afortunadamente fue cambiando en españa y también fue más complicado en españa cada vez más afortunadamente

ante quienes se querían saltar la ley nos fuimos dotando de herramientas para proteger la libertad de todos porque ustedes

señora gorizelaia señores de eh bildu y señores del partido nacionalista vasco

tiene exactamente los mismos y además tienen los mismos cauces y las mismas obligaciones para defenderlos que es la observancia de las leyes de las que nos hemos dotado

desgraciadamente es una ofensiva absolutamente irresponsable por parte de unos políticos independentistas a los que su pueblo a los que su ciudadanía les importa bien poco porque han hecho todo lo que han estado en su mano a lo largo de los últimos años

por enfrentarles por alentar el conflicto por echar gasolina en lugar de serenar en lugar de buscar cauces de entendimiento

en parlamentos o fuera de los parlamentos lo han hecho saltándose la ley y eso en españa en un estado democrático social y de derecho

y ustedes del partido nacionalista vasco deberían de saberlo también lamentamos profundamente aunque ya no es nuevo esta ofensiva independentista

a eh bildu junto al partido nacionalista vasco a propugnar no solo la ruptura del estado de derecho sino también lo que eso conlleva
la ruptura de la separación de poderes lamentable eskerrik asko sémper jauna

parlamentario poco hábil para intentar

la piedra y esconder la mano es decir vamos a apoyar esto pero poquito que no parezca que no se

la soga en la casa del ahorcado es verdaderamente sorprendente que usted mente como referencia de autoridad a aquel que a ustedes tanto les ha llamado la atención por aquello del todo es eta y todas estas cosas

avanzamos sorprendente mire en relación con el ciento cincuenta y cinco porque se ha demonizado y entiendo que es una bandera muy visible y muy fácilmente identificable que les

claro la aplicación del ciento cincuenta y cinco se activa desde el momento que quienes tienen la responsabilidad de gobernar con sensatez

a la ley su comunidad autónoma como es en este caso

igual que otros países de nuestro entorno igual que otros países de la unión europea

la constitución pero les voy a decir dos cosas la primera verdaderamente seria saben qué sucedió claro aquí cada uno tiene su experiencia vital obviamente y cada uno también pues responde a esto lo que pasa es que hay cosas objetivas saben qué sucedió en cataluña cuando se aplicó ciento cincuenta y cinco en una parte notable de la ciudadanía en cataluña alivio alivio porque cuando uno está gobernado por irresponsables incluso muchos nacionalistas quieren que eso cambie sabe y cuando uno está gobernado por quien solo tiene un objetivo en la vida que es generar conflicto

en cataluña con determinados movimientos sociales que reivindican a su gobierno que haga algo para aliviar determinados estragos por los que está sucediendo y su gobierno le dice oiga a mí qué me viene a hablar de salarios a mí hábleme de independencia

y hay un gobierno y en este caso un estado que aplica con rigor con seriedad y con proporcionalidad

eso provoca alivio porque aquí de lo que se trata es que las instituciones funcionen de que los servicios públicos se presten

y con eficacia de que el dinero que paga los ciudadanos a través de sus impuestos y que les cuesta un congo hacerlo tenga un resultado en su día a día en que los gobiernos hagan aquello para lo que se les paga pero cuando hay gobiernos que utilizan su responsabilidad política para otras cosas que es para dar rienda suelta a sus obsesiones particulares y eso redunda

y le aseguro que no descarta traer de regalo el ciento cincuenta y cinco a cataluña el año dos mil diecinueve si los independentistas

de vulneración de los derechos de todos los catalanes olentzero traerá el ciento cincuenta y cinco no le quepa a usted ninguna duda y sé que no la tiene muchas gracias eskerrik asko

nola vale

me gustaría hacer una introducción a la moción que presento hoy diciendo que hoy no vamos o al menos no es mi intención aquí en esta cámara si el eucalipto es una especie buena o mala per se no juzgamos a las especies porque las especies no son buenas o malas lo que juzgamos es cómo se comporta el eucalipto en nuestros ecosistemas cómo se comporta en nuestros montes no en los australianos sino en los vascos

el eucalipto aquí la realidad es que los eucaliptos en euskadi son perjudiciales son perjudiciales y tienen unas consecuencias medioambientales debate fundamentalmente medioambiental pero también sociales y económicas sin duda es una especie que aquí en euskadi es perjudicial kaltegarria da

egiten du cómo actúa el eucalipto para comportase cómo se comporta en euskadi

fíjense las hojas de los eucaliptos no se descomponen en euskadi no se descomponen porque en euskadi no hay ningún animal

no hay ningún invertebrado en euskadi que puede descomponer las hojas de los eucaliptos eso significa que no se pudren los eucaliptos no lo que sucede es que poco a poco a medida que se van acumulando van acabando con la cadena atrófica bien en los suelos bien en las aguas cuando van empobreciendo la cadena atrófica lo que sucede es que los suelos tienen una menor fijación de nitrógeno

debajo de un eucalipto los suelos se empobrecen siempre y no solamente se empobrecen sino que los eucaliptos como consumen muchísima más agua empobrecen y secan

para desecar marismas y pantanos no para producir madera para desecar marismas y pantanos vuelvo a reiterar aquí

es cómo se comporta la especie pues bien la hojarasca que no se descompone además desprende una serie de sustancias químicas el famoso aceite esencial de eucalipto que impide la germinación

el eucalipto impide la germinación de otras especies en consecuencia provoca la desaparición de líquenes y de otras plantas y con ellos desaparecen las aves

todo esto son datos basados en informes científicos así es como el eucalipto acaba con nuestra biodiversidad en nuestros montes pero nos queda la segunda parte cómo coloniza el eucalipto cómo coloniza bien

una especie de rápido crecimiento de muy rápido crecimiento

en veintitrés años cuatro hectáreas de eucalipto se

aproximadamente duplica su superficie cada año y medio pero tiene otra técnica que utiliza muy a menudo y es

resiste al fuego sus raíces y sus semillas necesitan del fuego para germinar

de hojarasca y de aceite esencial altamente inflamable de eucalipto que ha llevado a que los bomberos de australia lo hayan denominado el árbol de la gasolina

es que crea las condiciones necesarias para que se produzcan los incendios

por eso los incendios más virulentos se producen cuando hay eucaliptos por medio

claro qué sucede en euskadi que los eucaliptos van avanzando

de la superficie arbolada del lemoiz el setenta y cinco por ciento

en muskiz el sesenta en bakio más del cincuenta en bermeo el cuarenta y uno y en busturia el treinta y cinco por

y no siempre porque lo planten propietarios forestales

como he dicho y esto es una afirmación científica no es política ni es una idea esto significa esto significa

tenemos que tener en cuenta las afirmaciones unánimes de la comunidad científica adoptamos

en el ámbito técnico y en el ámbito institucional

diecinueve científicos y científicas expertos en la materia declaró unánimemente

que efectivamente todas y cada una de las variedades de eucalipto tiene un carácter invasor y decía además

todas y cada una de las especies en el catálogo español de especies exóticas y además recomendaba extremar la precaución con nuevas introducciones y plantaciones

siempre que se observen naturalización de cualquier especie de eucalipto en nuestro territorio

esto decía el comité científico dependiente del ministerio de agricultura obviamente el ministerio de agricultura

no hizo caso a la recomendación científica de su comité científico encargó un contra informe a un ingeniero forestal

echó abajo la solicitud que había de inclusión

pero eso no acaba con el problema negar la evidencia y mucho más negar la evidencia científica no termina con el problema lo estamos viendo con el cambio climático

nos lleva a nada lo que nos lleva a algo es hacer caso a los científicos y científicas ese mismo comité científico

los eucaliptos porque todas las especies que analiza ese comité científico se hace una evaluación midiendo del cero al veintinueve cuál es el grado

del cero al veintinueve fueron calificadas con un veintiséis con un veinticuatro

no es solamente es que sea una especie invasora sino que es una especie muy invasora

en fin tenemos la capacidad en euskadi que nos da

de decidir qué hacemos en política forestal de decidir qué hacemos con un eucalipto qué hacemos con un pino tenemos esa capacidad igual que lo tiene la junta de andalucía

en el catálogo de especies invasoras de andalucía sino que además está llevando a cabo actuaciones de eliminación en zonas prioritarias con control poblacional

nativas lo está haciendo la junta de andalucía lo está haciendo el partido socialista obrero español mientras le dejen seguir ahí tenemos

hay una enmienda a nuestra moción presentada por el partido socialista y por el partido nacionalista vasco a la cual no nos vamos a oponer a hacer otros estudios pero lo que estamos haciendo es perder el tiempo

darle vueltas al mismo tema para no hacer nada y mientras no cambiemos la política forestal en nuestras instituciones sucederá como en ese relato breve

que decía algo así como cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí hoy vamos a votar nuestra moción

y posiblemente esta moción no saldrá adelante y lo importante no es que salga adelante esta moción lo importante es traer el tema aquí al parlamento tomar conciencia de lo que está sucediendo

y luego a partir de ahí decidiremos si seguimos durmiendo o no pero como en el cuento de monterroso cuando despertemos el eucalipto seguirá ahí y será cada vez más grande y en un momento dado a lo mejor lo que nos hace despertar

como no se conoce hace tiempo y entonces habrá mociones aquí en este mismo parlamento

pidiendo medidas pidiendo planes de gestión forestal pidiendo planes contra los incendios cuando ahora hoy tenemos la oportunidad de empezar a avanzar

termino ya diciendo que el eucalipto no solo que haya menos diversidad nos hace más pobres nos hace más pobres como sociedad y económicamente primero porque es una especie

pero además nos hace más pobres porque la biodiversidad el respeto al medioambiente es riqueza mientras no lo entendamos

que económicamente es más ventajoso plantar dos hectáreas

entonces como sociedad estamos condenados a ser cada vez más pobres nada más muchas gracias eskerrik asko becerra jauna

a todos el pasado diecinueve de octubre ya el señor arriola explicó en el pleno de control a través de una interpelación la postura del gobierno vasco en lo que tiene que ver con este asunto es verdad que no compartimos en el cien por ciento lo que plantea el señor becerra pero tampoco lo vemos desde un punto de vista casi

dictamen que formaba parte como usted sabe de un procedimiento que concluyó con la desestimación de la solicitud de inclusión del eucalipto

existen posicionamientos diferentes como el de la subdirección general de política forestal del propio ministerio el de expertos que han

y tal y como reconoció el propio consejero es verdad que hay que tener en cuenta los diferentes puntos de vista pero no se puede negar la situación de que existen por otra parte hay normativa que es importante atenderla antes de elaborar un criterio y de hacer una defensa o una crítica de este asunto concreto la ley de patrimonio natural y de la biodiversidad

y el real decreto seiscientos treinta barra dos mil trece de dos de agosto que regula el catálogo español de especies exóticas invasoras

sustituye al anterior que ya fue anulado en los tribunales y no podemos olvidar el reglamento de la unión europea mil ciento cuarenta y tres barra dos mil catorce

el inventario forestal del país vasco dos mil diecisiete los eucaliptus están aumentando su superficie año tras año y eso una realidad actualmente ya alcanzan

entre dos mil once y dos mil dieciséis en el año dos mil nueve se publica el diagnóstico

elaborado por especialistas en botánica de la universidad del país vasco por otra parte no se puede negar que son varias las fuentes que consideran a una o varias especies del genero eucaliptus como especies exóticas invasoras naturalizadas y recomiendan su inclusión en el catálogo español de especies exóticas invasoras los dictámenes del comité científico asesor del comité de flora y fauna silvestres

y en el dos mil diecisiete para todas las restantes

desarrollada por la comisión europea incluye en su listado quince especies de eucaliptus tres de ellas

y el resto bajo o desconocido pero es verdad que su iniciativa era muy concreta y aunque quizás la necesidad de estudiar la situación podíamos estar de acuerdo no tanto en el planteamiento que usted hacía

debiera ser una cuestión técnica así de la misma manera que el comité científico del ministerio dictaminó el carácter invasor de distintas variedades como le he dicho ahí está la opinión de la subdirección general de política forestal del propio ministerio

se debiera ver equilibrada con el equilibrio ambiental y nuestro patrimonio natural en lo que tiene que ver con su punto dos en lo que nos hablaba de promover una política forestal que impulsara la recuperación de nuestros bosques es verdad que

elkarrekin podemos pero también creemos que no debiéramos de llevarnos a juicios de valor previos antes de tener ese estudio

los dos departamentos afectados tanto medio ambiente por la parte de biodiversidad

como queda claro pero también hay que tener en cuenta la opinión del departamento de desarrollo económico porque es el competente en la materia de política forestal

biodiversidad establece efectivamente que las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales podrán establecer catálogos de especies exóticas invasoras determinando las prohibiciones y actuaciones suplementarias que se consideren necesarias para su control o erradicación las comunidades autónomas podrán incluir

lo que consideren necesario a la hora de prohibir o de permitir esta creación conlleva su creación como mínimo mediante decreto legislativo del gobierno vasco en la actualidad como todos ustedes saben se está tramitando el ante proyecto de ley de conservación de patrimonio natural que en su artículo setenta y tres crea

por lo que respecta al punto dos de la moción únicamente instar a que entre todos podamos contar

que también atienda este asunto y en el que espero que todos podamos estar de acuerdo

lo que debiera abordarse es la realidad de la afección del eucalipto en nuestro territorio

biodiversidad no a partir de la situación de otros territorios cercanos como es galicia o portugal aunque se puede estudiar como

tenidas en cuenta pero no que a partir de ahí euskadi tenga que tomar una decisión en uno u otro sentido por lo tanto creo que este es un tema que no sé por qué me da que no va a ser la última vez del que se va a hablar

se está trabajando en el ministerio afectado tenemos leyes que se van a poder tratar en el parlamento vasco espero que en un breve espacio de tiempo y que probablemente tenga que incluir algo sobre este asunto en alguno de sus artículos y lo que creo es que debemos invitarnos todos al debate a intentar acordar

nos une a todos por tanto votaremos en contra de la iniciativa del señor becerra es cierto que hay un punto compartido entre su iniciativa original y la enmienda

mantener nuestra enmienda es el motivo por el cual votaremos en contra de los puntos que usted ha planteado nada más muchas gracias

pero sí voy a intentar explicar por qué estamos en contra de su moción que básicamente habla de que hay que declararla exótica e invasora

aunque la iniciativa origen en aquella interpelación usted hablaba de que como se van a morir y se van a quitar miles de pinos millónes de pinos va a entrar el eucalipto y claro el punto de partida es erróneo

veremos lo que ocurre con el pino veremos qué invierno ocurre qué tratamientos cómo evoluciona la enfermedad pero el pino no se muere con esa enfermedad no hay porqué quitarlo y la segunda es porqué necesariamente va a sustituirlo por el eucalipto cuando digamos

que pueden sustituir y que a veces han sustituido al eucalipto es decir

no es cierto que es algo que usted normalmente lo utiliza mucho

pide una retirada un asesinato preventivo del eucalipto les gusta mucho

que al eucalipto y no mire primero vamos a demostrar las cosas vamos a esperar qué ocurre con el pino qué va ocurriendo pero es que además

exótico e invasor y otra cosa es que medioambientalmente no le guste

son dos cosas distintas porque el real decreto que establece cuál es la característica de invasor expresa muy bien el tema porque exótico oiga exótica es y mucho

vamos a continuar contextualizando realmente el bosque vasco

sabe lo que es el monte el bosque en euskadi es el cincuenta y cinco por ciento de la superficie de euskadi el cincuenta y cinco por ciento las frondosas de ese cincuenta y cinco son el cincuenta y tres coma cinco

de todo eso son plantaciones y el cuarenta y ocho bosques naturales es decir tenemos según el último inventario forestal el del dos mil dieciséis

para mí equilibrado entre coníferas frondosas cultivos y bosques ahora sobre si es equilibrado o no cada uno tendrá su opinión lógicamente

de la superficie arbolada de euskadi básicamente concentrada en el área costera de bizkaia en álava hay solo setecientos veinticuatro y en gipuzkoa sabe cuánto

eso es lo que tenemos de eucalipto ahora entremos en el meollo de la cuestión que usted

e invasora exótica lo es lo es lo reconozco confesión como el ochenta por ciento de la flora que nos circunda señor becerra el ochenta por ciento

exótico es la patata y es el tomate el problema es que el decreto establece

y lo importante es que se expanda fuera del entorno donde está y el eucalipto además de ser exótica es cultivo

es un cultivo y hay científicos hay muchos más estudios a favor

mire si usted ve en el campo un eucalipto fuera de su plantación

lo mismo estarían invadiendo exactamente igual el problema es

de greenpeace su alimento ideológico básico en estas materias que dice

hace falta alejarse de ámbitos universitarios y de investigación condicionados por las empresas papeleras debiendo de decirse lo mismo de los detractores del eucalipto es decir hay apasionamiento hay subjetividad y la ciencia la está pervirtiendo en muchos casos y sobre todo en el tema del eucalipto es un problema demasiado ideologizado

el informe famoso que se hace de los expertos al ministerio

que dice que efectivamente es así voy a decir en cualquier caso una frase están estudiando que sea exótica invasor y dice y dice en la frase espere que la busque

una especie puede considerarse invasora no solo por su capacidad de dispersión y colonización

con un par a ver o es su capacidad de dispersión o es su impacto ambiental

de su dispersión esa misma autora que le he dicho de este informe al año siguiente con otra gran experta hacen un estudio profundo

y llegan a la conclusión de que no hay dispersión de que no pueden demostrar la misma autora por eso digo que

pero si somos sinceros honestos y cogemos todos los estudios y los juntamos vamos a tener un conflicto mire si este parlamento hubiera existido hace dos mil quinientos años que podría haber sido

incluir en el catálogo de especies invasoras a la haya fagus sylvatica

que no se utilizaba para ningún tipo de cultivo maderero y desplazó

disminuyó notablemente la biodiversidad de su sotobosque apostaría usted en aquel momento

es y mucho no voy a criticar al haya pero es y mucho y hay estudios científicos que lo demuestran hay un estudio científico de un señor catedrático

las dos facetas posibles que se pueden analizar y él viene a decir que el remplazo de bosques nativos por eucalyptus supone en la indivisión en la descomposición de la hojarasca una indivisión del veintidós por ciento es decir

hacía el bosque natural mientras que si el remplazo del bosque lo hace el haya

yo me puedo quedar con este dato de este trabajo y seguir luchando por ese aspecto pero no es así porque habrá otros datos de otro tema

y los incendios mire los grandes incendios forestales de euskadi fueron en diciembre de ochenta y nueve y sabe lo que se quemó pino marítimo sabe lo que está pasando por ejemplo

que había el mayor bosque de pino silvestre de euskadi

el haya por qué porque no hay ganado ha desaparecido el ganado ya no comen brote del haya y el haya está acabando con el pino es invasor sí

pero la política forestal es mucho más compleja que coger un dato una sensación y trasladarla y yo desde luego creo que

del mundo está cubriendo algunas facetas de algunos montes para por lo menos tenerlos cubiertos de árboles y sin ser un gran detractor del eucalipto ni tampoco un gran defensor creo que tenemos que analizar las cosas razonamiento lo que sí le voy a decir y eso nadie me lo va a cambiar es que el eucalipto es exótico como el primero

para nada ni nadie va a demostrar que el eucalipto es invasor por tanto la clave de lo que usted ha traído inicialmente aquí

forestales la clave que ha traído usted aquí que era incluirlo en un catálogo de especies exóticas invasoras decae por el concepto mismo de lo que es ser
invasor aunque no le quitaré jamás que sea exótico muchas gracias eskerrik asko tellería jauna zuzenketak aurkeztu

desde el grupo popular vamos a votar en contra de la iniciativa presentada por el grupo elkarrekin podemos la iniciativa que presenta en el primer punto dice lo siguiente esta cámara debe considerar que la presencia del eucalipto en nuestros bosques y terrenos forestales altera su biodiversidad

su capacidad de regeneración su vitalidad y su capacidad para satisfacer ahora y en el futuro funciones ecológicas y sociales importantes ahí es nada todo esto así a bocajarro

sin datos de contraste sin referencias ni comparaciones estigmatizando el eucalipto y prohibir lo que les gusta prohibir de verdad

prohibir sin una justificación sin un dato solo hace referencia a una recomendación

recomienda incluir las distintas variedades en el catálogo de especies

de sus características biológicas fisiológicas y ecológicas

lo que le da pie al señor becerra a solicitar que en la comunidad autónoma se cree también

rojo tanto en noviembre del dos mil once cuando se crea el catalogo español de especies

que fue recurrido que hubo una resolución judicial y que fue

en el que el primer catálogo contenía dos especies

a dos especies exóticas de eucalipto y en el nuevo catálogo pues no aparecen lo que sí aparece en el catálogo de especies exóticas e invasoras son ciento ochenta y seis especies en el país vasco se identificaron

y que fueron incorporadas a los distintos a los diagnósticos que se hacen en el gobierno en nuestro territorio como especies invasoras y no está el eucalipto no hace la iniciativa ninguna referencia

a lo que la unión europea en el dos mil catorce aprobó el reglamento sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies

en dos mil dieciséis se aprobó el listado de especies

y usted no hace ninguna referencia por qué utiliza como eje de las políticas objetivo principal lo que propone la unión europea y en este caso no no le interesa lo que dice la unión europea en este caso sorprende

si en el listado europeo de especies invasoras no aparece

invasora ni en el catálogo español tampoco por qué tiene que aparecer en el catálogo vasco por qué cuál es el argumento no nos da un argumento

europea hay una cosa de ese comité que utiliza usted como documento de cabecera para esta iniciativa donde se dice en su final se recomiendo extremar la precaución con nuevas introducciones y plantaciones

y llevar acabo medidas de erradicación antes de que se produzca la invasión siempre que se observe naturalización

todo lo que ha dicho el comité no vale y como ha dicho el señor tellería esto hoy por hoy no se ha demostrado por lo tanto lo que dice el comité solo tiene sentido si se observa la naturalización si se ha adaptado si se reproduce en el mismo espacio por lo tanto

en nuestro territorio no hay ese peligro ni en ningún otro sitio

no hay un estudio hoy por hoy ni en portugal que se han hecho muchos y aquí portugal con científicos de ambos

territorios no se ha hecho ningún informe que diga que existe naturalización por lo tanto lo que dice el comité

para generar un relato como hacen siempre luego hacen una serie de eslogan alrededor de ese relato y lo publicitan y en eso estamos en publicitar lo que ya han reproducido en otros sitios como galicia

es ese el objetivo de la iniciativa el eucalipto les importa

un comino porque el relato está totalmente pervertido y el informe del comité lo dice

hay que llegar hasta el final y dice todo esto tiene sentido

si se observa naturalización por lo tanto si hoy por hoy no hay ningún informe que demuestra naturalización lo que dice el informe del comité

tiene sentido está ahí pero nada más no justifica lo que usted ha traído aquí y por qué

tienen bajo peso son pequeñas y tienen baja capacidad para dispersarse

y es esto lo que determina el carácter invasor y es esto lo que el comité lo dice de manera velada es verdad pero que lo dice

como le decía solo es posible en suelos con una ausencia total de competencia vegetal y con una capa mineral al descubierto que le de la luz es decir que la naturalización de la especie solo prosperaría en un terreno desnudo con el horizonte

y sin esta capacidad tal y como dice el comité es difícil imputarle el carácter invasor por lo tanto señor becerra estamos en eso

hablaba de la hojarasca y es verdad y lo ha dicho también el señor tellería la hojarasca que genera el eucalipto es de mala calidad pero la producida por las hayas

y fíjese tenemos cincuenta y cuatro mil seiscientos diecinueve hectáreas de hayas

y no le ha preocupado el haya le ha preocupado el eucalipto por qué porque estamos en el relato del eucalipto no estamos en el del haya no toca pero seguramente tiene o provoca tantos perjuicios a la biodiversidad

seguro hay un relato y usted lo conocerá hacía mención

ya existía hace años y no estamos llenos de eucaliptos ya existía hace mucho tiempo y usted conocerá que son famosos los eucaliptos del souto da retorta

que ocupan tres hectáreas alcanzan ochenta metros de altura los seis arboles más antiguos fueron plantados entre los años mil ochocientos ochenta y cuatro y mil ochocientos ochenta y cinco por un

la erosión del río landro para drenar los terrenos fíjese

que deseca los terrenos oiga que no fíjese para qué los plantaron y que no son de ayer que llevan un siglo o más por lo tanto señor

becerra que veo

en el relato de cómo generar

y agitarla en cuanto a la enmienda que presenta los grupos del gobierno me sorprende la enmienda por un lado

y que nos van a arreglar el mundo pues me pide la señora rojo fe y yo no le concedo fe luego en el segundo punto nos dice que el parlamento insta a los departamentos a un estudio científico y técnico que evalué la situación del eucalipto hombre me gustaría que lo encarguen a la comunidad científica

hacer un informe científico y luego dice la tercera que

que insta al gobierno vasco a trabajar con el resto de instituciones competentes en el impulso de las políticas medio ambientales más adecuadas para la protección de nuestro territorio y biodiversidad dos años de gobierno y parece ser que tienen que seguir ustedes insistiendo a sus responsables que no se han debido

para trabajar para trabajar con las instituciones competentes para trabajar en el impulso de las políticas medio ambientales que sean adecuadas

biodiversidad dos años de gobierno y les tienen que seguir insistiendo en esto les tienen que seguir insistiendo en esto pues me están dando un poco de pena la verdad mire algunos se preguntan algunos se preguntan qué podríamos hacer un gallego decía qué podemos hacer qué hacemos con la camelia

que viene de china qué hacemos con la almeja japónica cubre las rías qué hacemos con nuestros vinos que se maceran
en barricas de roble francés qué hacemos amaitzen joan mesedez

la vaca frisona que ha desplazado a la rubia gallega qué hacemos con todas esas variedades razas que han venido de fuera qué hacemos con ellas señor becerra nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz anderea

gorakada esango nuke nik la famosa banda marrón y roja esta que están sufriendo los pinos parece haber activado las alarmas en cuanto a otras especies no solo se han activado las alarmas se han activado también los riesgos pero cómo no también las oportunidades y oportunidades también de negocio

las enfermedades en los pinares cuando las alarmas se han activado y nos ha entrado un miedo nos ha entrado un miedo no solo a lo que estamos sufriendo sino a lo que está por venir

la foto es muy sencilla la de colores es a rayas roja y marrón la económica en números rojos y la política pues la verdad

una fotografía en rojo y marrón a consecuencia de la famosa ya enfermedad de los pinos que no somos capaces ni de dar una solución

sirvan de algo una fotografía económica como decía en números rojos

y una fotografía política gris porque las diferentes administraciones han sido y son incapaces

sino también a la salud de las personas de los acuíferos de los montes son incapaces de dar una solución a un sector

pero siguen sin dar una respuesta efectiva a la gestión de los montes y al sector con un gran peso económico

un modelo de política forestal dirigido únicamente a sacar rentabilidad de los montes y durante años se ha conseguido es verdad pero llega un momento que la rentabilidad económica

no sirve que valgan dinero los pinos no sirve que los eucaliptos valgan dinero no sirve en pocos años podemos ver los montes desnudos sin árboles y entonces la rentabilidad social

ya seguramente será tarde y encima nos la habremos cargado la evolución de las plantaciones de eucaliptos para sustituir pinos está siendo incluso peligrosa y va a acabar siendo dramática

dramática también es la política forestal cercana incluso diría que de algunas administraciones cercanas

por eucaliptos y no solo propone sino que además los incentivan vamos a hacer una política forestal consensuada qué menos respetuosa

como dicen y cautelosa hoy hablamos de una especie que va a crear

está demostrado que estas plantaciones intensivas son perjudiciales a nivel mundial y no nos olvidemos de los incendios de galicia de portugal

está demostrado que las plantaciones de eucaliptos son perjudiciales secado de suelo eso no lo digo yo

pérdida de biodiversidad en la fauna en la flora un cultivo de ciclo muy corto sí muy corto pero económicamente también muy goloso

tenemos que buscar una rentabilidad también social y medioambiental y hoy en día ni una cosa ni la otra la creación del catálogo de especies exóticas e invasoras entendemos que es necesario es más en su propuesta está incluida en las dos

porque aquí quienes verdaderamente son invasoras no suelen ser todas las especies bueno sí tenemos una especie especialmente invasora que es la especie humana

a tope las personas que por intereses económicos invaden planifican hacen y ponen en marcha políticas insostenibles que lo estamos viendo que ponen en riesgo los montes pero no solamente los montes ponen en riesgo todo lo que rodea los montes estas personas son las verdaderamente invasoras

y es lo que nos espera como no pongamos urgentes medidas sabemos las causas además

podríamos nombrar unas cuantas de lo que nos espera y las causas

es sencillo falta de ganado lo acabamos de oír efectivamente

está desapareciendo despoblación el medio rural se vacía gestión deficitaria y cortoplacista de las administraciones

incluso diría políticas forestales solo ineficientes y la propiedad de los montes

unos montes públicos bien gestionados garantizan que haya personas que participen en esa gestión y que no todo el interés privado busque el beneficio económico

yo diría que incluso clientelismo por encima de intereses ambientales y sociales

nosotros estamos dispuestos a trabajar pero también vamos a poner medios encima de la mesa no hay medios no existen plazos y desde luego las herramientas técnicas y humanas

no están dando sus frutos desde eh bildu estamos de acuerdo en la puesta en marcha del procedimiento administrativo para crear este catálogo de especies exóticas e invasoras nos parece importante hacer el estudio que

no estamos diciendo que los profesionales que trabajan para el gobierno y los departamentos no sean profesionales pero siempre independiente va a garantizar

hay que ponerse unos plazos si no estamos acostumbrados a presentar aquí mociones propuestas que luego se quedan un poco en los cajones y a los que parece que nadie le interesa sacarlos

entenderíamos acertado plantear una moratoria una moratoria a la plantación de eucaliptos hasta que no sepamos los resultados de los estudios y hacia dónde vamos en esta política

voy a acabar nosotros desde luego ponemos en duda el modelo agroforestal hace aguas ya y desde luego vamos a intentar cambiarlo pero la sorpresa de hoy ha venido cuando en dos mociones prácticamente parecidas dos propuestas en las que puntos coinciden enteros no sean capaces ustedes de llegar a un acuerdo a una enmienda transaccional eso sí que nos sorprende

no voy a intervenir en la réplica he sido breve creo que he cumplido las dos cosas que todo el mundo dice por aquí y luego nadie cumple vamos a votar

el medio rural y también los pueblos se merecen sobre todo el sector también se merece que nosotros aquí nos pongamos de acuerdo eskerrik asko eskerrik asko

señora presidenta consejeros consejera señorías buenos días bien estamos en el último punto del último pleno del año y vamos a

a alcanzar un acuerdo en relación con un tema muy importante que es hablar de los medicamentos genéricos y los biosimilares y hablar de su potencialidad y sus planes de futuro desde luego

seré breve y es que ya hace un año

en relación con la salud en relación con la medicina hablábamos de la medicina de precisión con la medicina personalizada la medicina genómica en relación con ese ámbito de futuro que va a tener ayer también hablábamos de eso y ayer efectivamente

oncológico para los próximos años y que tampoco se hablaba estrictamente de medicamentos ni de fármacos pero también en esas dos cuestiones en el desarrollo de esa medicina personalizada medicina de precisión y del propio plan oncológico la farmacia y desde luego los medicamentos son

elemento esencial además sin ir más lejos ahí están los acuerdos y las actuaciones de la sociedades

de las sociedades de farmacia hospitalaria en relación con la importancia que tiene seguir potenciando seguir informando sobre todo en relación con el uso de los medicamentos los genéricos son

los biosimilares son algo que hay que seguir potenciando sobre lo que hay que seguir informando y sobre lo que hay que actuar estratégicamente por eso nosotros pedíamos que es necesario buscar medidas que potencien el uso de genéricos y así como el uso de los

y por ello nosotros entendíamos que la comisión de farmacia del consejo interterritorial del sistema nacional de salud debe elaborar o se debe elaborar en ese marco o a quien corresponda un plan estratégico hablábamos de un plan estratégico bueno luego podrían ser dos pero

mejorar el sistema buscando los instrumentos que potencien y mejoren la calidad asistencial y la competencia en el sector

en relación con lo que ha sido la enmienda de transacción se habla de dos planes estratégicos uno para cada tipo de medicamento bien ahí está el debate que puede estar bien el asunto es lo importante y lo necesario es esta actuación estratégica sobre

sobre estos dos tipos de medicamentos que lo que han hecho ha sido revolucionar la atención sanitaria y la promoción

en la población y en la lucha contra la enfermedad eso es lo

sistemas de salud también en el futuro sin duda contribuirán los medicamentos similares

son además cada vez más importantes el envejecimiento de la población la cronicidad de las patologías el incremento de los precios de los medicamentos biológicos de las tecnologías sanitarias situaciones que provocan día a día constantemente

hay que apostar por esas herramientas genéricos medicamentos biosimilares

una de las herramientas son los medicamentos genéricos y biosimilares por lo tanto es imprescindible en este momento seguir impulsando este tipo de medicamentos y hay que aprovechar el potencial que ambos grupos de medicamentos tienen y

al sector un marco de estabilidad que les dé seguridad jurídica por eso estamos hablando de que hay que actuar jurídicamente políticamente profesionalmente

un plan estratégico o de planes estratégicos en relación con estos

deben contemplar desde luego una serie de medidas que cuenten con la participación de lógicamente las sociedades científicas de los profesionales sanitarios

y también cómo no de los pacientes nosotros presentamos una proposición no de ley que hablaba de un plan

parlamentarios sus aportaciones sus aportaciones vía enmienda de totalidad o vía enmienda de adición como ha hecho el grupo elkarrekin podemos y

explicar brevísimamente qué es un medicamento biosimilar es decir

según la agencia europea del medicamento un medicamento biosimilar es un medicamento

el medicamento de referencia cuya patente ha caducado el principio activo de un biosimilar y su medicamento de referencia es esencialmente la sustancia biológica

al igual que en el medicamento de referencia el biosimilar posee un grado de variabilidad natural y la agencia

y la seguridad de estos medicamentos y se autorizan cuando se han demostrado que la variabilidad y las diferencias

la fármacovigilancia y la vigilancia sobre esos medicamentos es absoluta

están perfectamente incluidos ya en lo que es la hoja de ruta de la actuación de la actuación médica la actuación sanitaria la gran pregunta son los biosimilares igual de seguros que los medicamentos de referencia con las garantías

biosimilares o de referencia deben prescribirse por marca para asegurar la trazabilidad es decir para esa vigilancia en relación

con el medicamento y ese es el elemento fundamental es decir estamos hablando de un instrumento de futuro estamos hablando de un instrumento que va a funcionar como los medicamentos actuales

costes en relación con lo que es un coste tremendo en la sanidad pública en la salud que es la farmacia y los medicamentos y vuelvo a decir que esta cuestión está apoyada por las sociedades

las sociedades médicas las sociedades farmacéuticas sin ir más lejos la sociedad española de hematología

en ese sentido bien entonces hemos alcanzado una enmienda de transacción es decir ya sabemos que en otros foros hay un debate sobre si debe de haber un plan estratégico o deben de ser dos o debe de ser uno sobre genéricos porque todavía el de los biosimilares no está muy claro qué es lo que hay que hacer o lo que hay que actuar bueno nosotros entendemos que tiene que haber también plan estratégico en relación con los biosimilares

el parlamento vasco insta al departamento de salud del gobierno vasco a que continúe

de farmacia sabemos que lo está haciendo es bueno hacer esta referencia de todas maneras porque hay que llevar un impulso de estas características

la elaboración junto con las comunidades autónomas eso está claro de un plan estratégico

lo que sí que tenemos que decir es que así como un plan estratégico de impulso para los medicamentos similares para su aprobación en el consejo interterritorial del sistema nacional de salud de las enmiendas hemos aceptado y desde luego se ha incluido

una enmienda del señor uria que hablaba de los profesionales y de la información

en este plan estratégico y en esta actuación y así entonces así décimos que asimismo considera que estos planes estratégicos deben contemplar acciones específicas de información actualización

a quién a los médicos del sistema de salud tanto además los que desarrollan su actividad laboral en la atención primaria de salud para su conocimiento como fundamentalmente claro los que

daremos un impulso trasladando esta iniciativa a quien corresponda

al consejo interterritorial para que vea que nos preocupamos también sobre esas cuestiones que son elementos de futuro después de haber abordado debates o propuestas o planes

oncológico para los próximos años o el que abordamos hace un año con la medicina

compañeros y compañeras parlamentarias muy breve voy a salir sin papeles porque hay

la primera cuestión elkarrekin podemos aprueba apoya y saluda la propuesta del parlamentario barrio acerca de que haya un plan estratégico

y un plan estratégico sobre biosimilares a cargo del consejo nacional del medicamento que el consejo interterritorial lo apruebe y que osakidetza lo ponga en práctica dicho esto tres ideas

son aves de rapiña que solo buscan el incremento de los sueldos de los miembros del consejo de administración

y están detrás de todos nosotros y nosotras de parlamentarias de políticos de dirigentes de miembros de la agencia nacional del medicamento por lo tanto esta propuesta que es correcta tal como está planteada tiene que tener cuidado y salir del mundo

y perverso de la influencia de las multinacionales farmacéuticas

no se pueden ni imaginar cómo campan a sus anchas en estos asuntos segunda idea quien prescribe son los médicos y las medicas del sistema

introducir esta enmienda de transición una cosa es su autorización otra cosa es su incentivación

pero otra cosa es la prescripción de los médicos y las médicas de nuestro sistema que no tienen información aún sobre biosimilares confianza formación actualizada

nosotros creemos que es fundamental que el diseño estratégico de este plan tenga en cuenta a los médicos y las médicas del sistema para que se actualicen en la utilización fundamentalmente de biosimilares que sin duda

introducen procesos de competencia y bajada de precios cosa que vamos a esperar y lo vamos a ver entre un veinte y un cuarenta por ciento han bajado los precios en la utilización

más utilizados en algunos estudios que conocemos y tercera idea y acabo en el proceso de información formación autorización

o en el conjunto del sistema de salud fundamentalmente hospitalario no

que todo lo pervierten la administración pública y nuestros dirigentes que tenemos dirigentes cualificados de sobra en el departamento de salud

informar formar actualizar e incentivar en el uso de genéricos y en el uso de biosimilares a nuestros profesionales nada más

con los medicamentos biosimilares y con los medicamentos genéricos este debate ya se suscitó además en madrid me parece que en el senado en dos ocasiones yo creo que los grupos parlamentarios aquí presentes estamos defendiendo lo mismo que en aquel momento defendieron nuestros compañeros en aquella cámara

entendemos que es fundamental en lo que tiene que ver con el planteamiento que nos ha hecho el señor barrio la estrategia en torno a los biosimiliares entendemos debe cumplir de dos requisitos el de calidad

en lo que tiene que ver con la voluntad de los profesionales además de la formación y de esta forma estén incentivados para poder prescribirlos pero no podemos olvidar también la aceptabilidad de los pacientes en lo que tiene que ver con estos medicamentos

y de la comisión permanente de farmacia y por supuesto en este caso y en este parlamento vasco la opinión

vamos a aprobar a través de la enmienda transaccional

como ya he dicho anteriormente los socialistas manifestamos en madrid una postura que venía

presupuestos generales del estado concretos que fueron los del año dos mil dieciséis por ello consideramos importante por un lado la elaboración de un plan estratégico de impulso de los medicamentos genéricos

medicamentos biosimilares creemos que es un tema importante que es un tema de calado para los profesionales para los pacientes y que creemos que además redundará

esos fondos para otro tipo de servicios por lo tanto creo que nada más que añadir felicitarnos por el acuerdo

los retos a los que se enfrenta al sistema sanitario son cada vez mayores con una población cada vez más envejecida

una realidad que requiere sin duda que se den pasos orientados a la adopción de medidas

sostenibilidad del sistema como puede ser efectivamente intervenir o actuar en el impulso y fomento

porque tampoco podemos obviar que uno de los mayores determinantes del gasto sanitario es la farmacia

garrantzitsua da osasun sistema publikoaren iraunkortasunerako faktore giza por su influencia positiva en la configuración y gestión

pero también porque repercute en una mayor accesibilidad para las y los pacientes a tratamientos ya que el fomento de estos medicamentos deriva también en mayores alternativas de tratamientos disponibles y posibilita el acceso a nuevas terapias biológicas

desarrollo de estrategias concretas dirigidas a promover la utilización de estos medicamentos sobre todo en un momento como el actual en el que los medicamentos genéricos bueno en cuanto a los medicamentos genéricos se está produciendo un cierto freno en cuanto

y respecto a los biosimilares bueno pues si bien llevan en el mercado ya una década es cierto también que su uso no está tan generalizado tan instaurado en niveles que se puedan entender como aceptables y en este sentido

como vengo diciendo compartimos la conveniencia de que en el marco de una planificación general de la política farmacéutica se avance en plantear estrategias

impulsar una adecuada información y conocimiento sobre estos medicamentos entendemos que es más eficaz que se desarrollen políticas específicas para cada uno de ellos porque las actuaciones que en su caso se deban de articular las estrategias para su incentivación serán diferentes por la propia naturaleza de estos medicamentos y por la

estamos pues ante dos realidades distintas existe una gran diferencia en su proceso de elaboración en el coste de su desarrollo en cómo se utilizan e incluso en su ámbito de actuación y creemos que estas diferencias es necesario tenerlas en cuenta porque van a afectar

para potenciar su uso y por eso entendemos que esto justifica desde nuestro punto de vista la conveniencia

diferentes porque creemos que de esta forma se asegurará mejor además su eficacia y en esta línea también está el departamento

ha impulsado la utilización tanto de medicamentos genéricos como de biosimilares y en aquellos foros en los que participa siempre ha defendido la elaboración de estrategias

que además va a ser apoyada por unanimidad por todos los grupos así que aprovecho para agradecer también la disposición

sí aprovechar para desearles a todos ustedes unas estupendas